decía que hoy traemos a debate una iniciativa de elkarrekin podemos consideramos que es de suma importancia para asegurar la igualdad real

hablamos de la gratuidad en la enseñanza obligatoria hoy hablamos del derecho a la educación obligatoria y gratuita gratuidad que ampara la ley y que los poderes públicos tienen la responsabilidad y la obligación de cumplir porque las leyes están para cumplirse y respetarse en este sentido

de asegurar el acceso universal y gratuito a la educación este gobierno debe hacer efectivo y real el derecho a la educación para todas las personas

independientemente de su origen social y de su nivel económico y por ello hoy traemos a debate esta iniciativa

ni más ni menos que garantizar la gratuidad de la enseñanza para todos y todas guztiontzako hezkuntzaren doakotasuna bermatzeari buruzko ekimena

qué estarán pensando las miles de familias que hoy nos están escuchando y que tienen la obligación de pagar la cuota mensual en los centros privados subvencionados concertados

para la educación de sus hijos e hijas las familias son realmente conscientes de que por ley no están obligados a pagar cuotas de enseñanza

es gratuita este gobierno informa debidamente a las familias de la no obligatoriedad del pago de cuotas de la enseñanza porque la ley

en varias veces en el parlamento impide de forma expresa a los centros concertados cobrar cuotas a las familias por la enseñanza

solo por servicios complementarios como lo son el transporte comedor actividades extraescolares o servicios psicológicos pero hasta ahí solo

porque como ya hemos dicho la educación es y debe ser gratuita para todos y todas esto tiene que quedar claro de una vez por todas y lo deben de conocer todas

debe facilitar de manera expresa a todas las familias especialmente a las familias que se encuentran dentro del sector socioeconómico más desfavorecido

porque las cuotas son una barrera que impide que esa mantra que tanto pp como pnv

de elección de centro ikastetxe aukeratzeko askatasunaren eskubidea y es aquí cuándo nosotros nos preguntamos

quién puede elegir centro qué familias pueden realmente elegir centro

quien no pueda afrontar el pago mensual de una cuota puede elegir centro

que quieren determinado colegio porque les gusta su proyecto educativo porque también quieren una educación sin dogmas con un currículo educativo sin contenidos confesionales dónde queda su libertad de elección de centro quién se lo asegura seamos responsables

no existe no es real ikastetxe aukeratzeko

los partidos que apuestan por la privatización de la educación para asegurar que la educación privada subvencionada o concertada se mantiene en detrimento de la educación pública la libertad de elección de centro no es más que la coartada perfecta

escolar porque sí la segregación escolar y la concentración existen en euskadi aunque este parlamento en su mayoría ni siquiera permitiese debatir sobre la segregación escolar la segregación escolar existe en euskadi y sino acérquense a muchas de las escuelas de vitoria gasteiz hablen con las ampa y con las direcciones de centro detrás

lo que realmente se esconde es el rechazo a la mezcla social a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase por lo que más que hablar de libertad de elección deberíamos hablar de opciones

y alumnas al estrato educativo que se corresponde con su origen social y no podemos permitir que las escuelas sean reflejo de las desigualdades sociales existentes en euskadi

irudikapena izatea la libertad de elección de centro

en el momento en que las cuotas voluntarias entre comillas

que quieran elegir un centro privado subvencionado puedan hacerlo por eso hoy a través del punto uno de nuestra iniciativa original instamos al parlamento

en todos los centros escolares sostenidos con fondos públicos instamos a este parlamento a algo tan sencillo como que se cumpla la ley

en el momento en el que por ejemplo todas las familias dispongan de la mismo

decidir en qué centro educativo matricular a su hijo o hija pero para eso deben de estar correctamente informadas y por eso en nuestro punto dos y tres instamos a este parlamento a que tanto en el periodo de admisión de solicitudes de matriculación

todos los centros sostenidos con fondos públicos todos proporcionen a las familias de manera prescriptiva en formato papel información donde se refleje la legislación y normativa vigente referida a la gratuidad de todos los centros

y que esta información esté visible sea accesible nos aseguremos de que se comunica y se informe a través de todos los medios visibles

irekia circulares etcétera etcétera pero que llegue

se asegura la libertad de elección porque desde elkarrekin podemos décimos que sí a la elección de centro pero para todos y todas y no es algo que digamos solo nosotras el propio consejo escolar de euskadi en sus informes periódicos

interesantes datos sobre la desigualdad y distribución de redes del alumnado becario al alumnado inmigrante del alumnado con necesidades educativas especiales del alumnado repetidor

y en el último informe referido al periodo dos mil quince dos mil diecisiete puede comprobarse que todos los estratos de la red concertada tienen un isec

superior a cualquiera de los estratos de la red pública con la correspondiente repercusión en los resultados académicos y también en las puntuaciones de las evaluaciones externas tales como pisa o las evaluaciones de diagnóstico

y rendimiento académico a tenor de estos datos el propio consejo escolar de euskadi ha venido realizando propuestas relacionadas con la equidad

o como que las cuotas por actividades complementarias sean aprobadas por la administración exigiendo en definitiva lo que ya está consagrado por ley

en todos los centros y para todo el alumnado básicamente porque todas las personas tienen derecho por ley a recibir una buena educación

es responsabilidad de este gobierno asegurar el derecho a la educación obligatoria y gratuita es simple es responsabilidad de este gobierno cumplir la ley sus propios decretos las familias deben de estar correctamente informadas existe un gran desconocimiento al respecto y también es responsabilidad de este gobierno para asegurar la libertad de elección de centro informar y comunicar a las familias al respecto

señor lehendakari señora consejera compañeros parlamentarios bueno vamos a ver yo cuando empecé a estudiar esta proposición

pues me alegré mucho porque el título prometía prometía el título era garantizar la gratuidad de la enseñanza en todos los centros escolares del sistema educativo vasco sostenido con fondos públicos no podemos estar

pero claro al leer la moción vi que la verdadera intención no era

en todos los centros sino prácticamente extinguir los que eligen la mitad de las familias vascas

y estoy de acuerdo con la representante de euskal herria bildu cuando ha dicho que la situación actual está agortua agotada y que es un tema urgente premiazkoa también estoy de acuerdo con ella pero bueno

primero espero que estemos de acuerdo en que los centros sostenidos con fondos públicos que ustedes suelen llamar

de iniciativa social es decir no estamos hablando de empresas

social lo que entra sale no son empresas bueno yo creo que el derecho a recibir una educación gratuita que está recogida tanto en la declaración de derechos humanos de mil novecientos cuarenta y ocho como en el convenio europeo de derechos humanos

en el artículo veintisiete creo que todos estamos de acuerdo todos la educación en las etapas obligatorias debe ser gratuita ya vamos consiguiendo más acuerdos

tuvo que interpretar ese artículo veintisiete y falló en mil novecientos ochenta y cinco en su resolución setenta y siete que

este artículo supone la obligación institucional de garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria en ambas etapas

que desean es decir que si un

eligen la educación concertada la institución tiene la obligación de

pero claro eso sucede hoy y no sucede señora consejera mire me da un poco

algunos le voy a dar eh voy a intentar cortarme pero vamos a ver

gasta por alumno un sesenta y tres por ciento más que la comunidad de madrid

entre lo que gasta la comunidad autónoma de madrid y lo que gasta el país vasco

navarra cataluña y sobre todo castilla león galicia aragón y asturias que tienen un entorno socioeconómico menor que el nuestro están todos por encima de la ocde en resultados de pisa y nosotros

pero en conjunto estamos por debajo y somos los que más dinero gastamos en educación por alumno pero eso tiene un truco eso es verdad hasta cierto punto porque en la educación pública el gasto por alumno ronda los nueve mil euros ronda los nueve mil euros y

no me corrija la consejera tengo los datos de dos mil trece en eso se gastó

pero claro vamos a la concertada que tiene las mismas obligaciones las mismas que está

elección de los padres que tiene derecho a la financiación pública según la sentencia del tribunal constitucional la libertad de elección de los padres señora macazaga

es una pieza estructural legal legítima de todo nuestro sistema no es un mantra y entonces qué sucede que claro que cuando hablan no porque el país vasco se gasta euros por alumno donde la mayor parte de las comunidades están alrededor de cinco mil cinco mil y pico no no es que no es verdad es que en la pública no es que se gasten siete mil euros es que

en la eso por ejemplo en dos mil trece les vuelvo a dar los datos se gastó

pero claro como hay que hacer la media con la concertada que ese año

dos mil dieciséis claro la media sale sale una media que todo el mundo en el resto de las comunidades y en el resto de europa

qué buena dotación no no será la pública

que es de iniciativa social que no son empresas no está financiada así

les he dicho que les voy a dar tengo aquí los datos de dos mil dieciséis de secundaria la concertada

por alumno recibió cuatro mil doscientos ochenta y cinco euros y la pública

pero la concertada está en cuatro mil doscientos ochenta y cinco euros

me estoy refiriendo a secundaria entonces todos ustedes han dicho aquí la ley hay que cumplirla la ley hay que cumplirla mire

capítulo en la que estamos de acuerdo la ley hay que cumplirla y los reglamentos etcétera etcétera y qué dice el reglamento vasco de los conciertos

detallarán para cada nivel de enseñanza el módulo de cuantía por unidad educativa

sostenimiento de los centros concertados de iniciativa social no empresas social

en dicho modulo se calculará igual que se hace en la pública los gastos de personal los gastos de funcionamiento ordinario los gastos de mantenimiento y conservación y los gastos de reposición de inversiones reales claro esto no se hace y yo lo siento señora consejera pero verdaderamente el sistema está agotado usted lo ve estamos teniendo huelgas y tenemos que repensarlo

como decían las personas que han intervenido antes que yo hay que cumplir la ley legea bete beharra da es obligatoria

cumplámosla mire en infantil volver a la financiación de dos mil nueve volver a la financiación de dos mil nueve

en ocho millónes de euros en ocho millónes de euros estos son datos del departamento de verdad porque en dos mil trece tenían

esto me parece que es para todo para la privada y la concertada en dos mil trece tenían

tuvimos un paso atrás fuertísimo lo que nos piden

los niveles de antes de la crisis pero luego además recordemos para iguales obligaciones iguales derechos y

la educación concertada de iniciativa social

de elegir vuelvo a repetir no son empresas no son empresas y tienen derecho a ser financiadas acorde con los derechos que se les imponen y sin agravios comparativos y eso es lo que tenemos que abordar

ni hablando de cuotas ni hablando de ese tipo de historias verdaderamente la educación obligatoria será

y será gratuita muchas gracias eskerrik asko de bengoechea

gracias presidenta hoy tenemos aquí una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario podemos relativa a garantizar la gratuidad de la enseñanza

sostenido con fondos públicos y es un tema importante tan importante que no entendemos cómo ustedes han tenido en el congelador esta iniciativa desde hace más de un año y la traen ahora precisamente ahora en este momento al parlamento un tema que era tan trascendente y tan importante como ustedes mismo decían sinceramente yo

que tiene un cierto tinte de oportunismos traer a debate esta iniciativa justo en este pleno y justo en el momento

concertada es casualidad pero hay pocas casualidades en política y no nos parece adecuado que en esta situación de huelga en estos centros se trate de usar este tema en un debate plenario cuando han tenido ustedes doce meses por delante para haberlo traído

y en esta proposición además ustedes tocan un poco todo sin realmente sacar nada en claro se toca el tema de la matriculación la responsabilidad del gobierno la inspección de cuotas el factor económico

que es que ustedes preferirían que se eliminasen los centros concertados y quiero decirle que nosotros nos somos partidarios de que haya una excesiva concentración en centro concertados preferiríamos

de la escuela pública creo que ustedes también pero es que la actual ley la que tenemos la ley de la escuela pública vasca y es verdad que es una anomalía en el concierto europeo y en el conjunto de españa reconoce una situación que viene dada por una situación muy específica que existía en euskadi en el momento de aprobarse dicha ley y a nosotros nos gusta respetar la ley

que se cambien es cierto como dice usted que la financiación de las cuotas denominadas cuotas voluntarias son difíciles

o de vigilar y mi grupo está a favor ya se lo avanzó de que esas cuotas se controlen adecuadamente y además es verdad que se puede decir que son ilegales puesto que no son obligatorias y esta cuota voluntaria es la que tendrá que vigilar el departamento

para llegar a un consenso que sea en beneficio de todos tomando un papel quizás de mediador y ese plan de inspección que ustedes plantean un plan de inspección específico

no vemos que sea necesario en este momento no consideramos que haga falta hacer un plan de inspección específico

puesto que al ser fondos de centros concertados y fondos públicos en este caso deberán de ser controlados y supervisados por la administración en todo caso podemos decir que la administración

eficacia debe hacer efectivamente que la normativa se visibilice y sobre todo que se haga respetar y se haga cumplir y de este modo la normativa se debe conocer

de forma adecuada y estamos de acuerdo que el momento de matricularse en un centro público debe ser público todo hasta la cuota y es cierto que a veces esta no suele aparecer o no se suele aparecer de la misma debe estar claro

qué es un centro gratuito otro tema después es el de las cuotas voluntarias por servicios complementarios pero este tema que ustedes plantean va más allá y lo que hay que garantizar de manera efectiva es la libertad y el derecho que tienen las familias a elegir libremente el centro y proyecto educativo no porque lo digamos los socialistas sino porque está expresamente recogido

y la primera problemática que existe y que es un factor a tener en cuenta y también influye es la baja tasa de natalidad que tenemos en euskadi una de las más bajas sino la más baja de europa en este momento y eso es un problema evidente también que hace se produzca una especie de caza de alumnos por algunos centros en algunas zonas

entre colegios públicos y concertados atendiendo a las demandas de los barrios alguien ha propuesto zonas únicas como la que se proponía en vitoria y nos parece que sería un problema de raíz puesto que con esta premisa lo que conseguiríamos es una situación

o a la desaparición de los mismos pero todo eso no se puede mezclar en una misma iniciativa y para un mismo debate cuando quien tiene clara la respuesta fundamentalmente es el gobierno

y es que cualquier centro o cualquier entidad sostenida con fondos públicos tiene la obligación de promover la igualdad y trabajar en contra de cualquier discriminación eso es lo que hemos defendido y eso es lo que pensamos que la educación hecha con criterios de racionalidad y equidad

la sociedad y ahí coincidimos en el planteamiento general con ustedes y con el grupo de euskal herria bildu ahora diferiremos en la forma de hacerlo efectivo y en la propuesta concreta nosotros hemos formalizado una enmienda con el partido nacionalista vasco en la que se hace

sobre admisión y escolarización del alumnado a supervisar se le insta a supervisar a través de las comisiones territoriales de garantía de admisión el proceso de admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados

territorial y a garantizar el cumplimiento de la normativa que lo regula sin perjuicio de las funciones y competencias de la inspección de educación es decir existen los instrumentos

y que funcionen no hace falta crear más planes planecitos campañas y campañitas

a trabajar a que se continúe con las actividades de inspección tanto desde las comisiones territoriales como desde la inspección educativa para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de las personas que conforman la comunidad educativa reconocidos por la normativa vigente y cómo no

también el derecho a las familias a elegir libremente el centro y proyecto educativo que quieren para sus hijos creo que hemos hecho una propuesta muy razonable muy centrada y que creo que aborda una solución del problema probablemente no de forma completa pero sinceramente

que lo que hay que hacer es ponerlos a trabajar me parece de una cierta irresponsabilidad

puntu hau al parecer estamos en el punto del orden del día en el que hablar un poco de todo y mucho de nada

aquí nada es casual en pleno plazo de prematrícula podemos una vez más alimentando la crispación la guerra entre redes y opciones de las familias cuanto peor mejor y tampoco nos sorprende porque lo tienen por costumbre en el ámbito de la educación y

eusko jaurlaritzak eta mundu guztiak el partido nacionalista vasco reconoce al sistema educativo vasco como un conjunto orientado para cubrir la necesidades educativas de las sociedad vasca

se realiza a través de dos redes complementarias y no subsidiarias que articulan el sistema educativo vasco los centros públicos y los centros y todos ellos forman a nuestro entender parte del sistema educativo vasco nadie duda de que la escuela pública tiene y debe tener un papel esencial y eso es obvio pero eso no justifica que haya quien menosprecie a la otra mitad del sistema educativo esto no justifica que se esté buscando y alimentando el enfrentamiento con el cincuenta por ciento de los alumnos y de las familias y el objetivo de algunos agentes políticos y sociales es claro que solo sobreviva la escuela pública

y el otro cincuenta por ciento del sistema de las familias del alumnado

que apuesta decididamente por un desarrollo humano con más equilibrio social en el que el estado de bienestar sea una prioridad

y entendemos la educación como un elemento esencial para promover la igualdad de oportunidades entre las personas y la construcción de una convivencia democrática solidaria y responsable

y en ese sentido entendemos que debe considerarse como un bien público que ha de desarrollarse en torno a elementos comunes como la equidad la convivencia la cohesión la calidad

a normas comunes en su ejercicio este parlamento avalaba esa concepción de bien público hace algunos meses cuando instábamos al departamento de educación

todos los centros educativos independientemente de su titularidad como suma de los valores y principios que informan y vertebran el sistema público vasco de educación

sobre la admisión y la escolarización del alumnado tanto en centros públicos dependientes del departamento de competencia en materia de educación como en centros privados concertados ya prevé

no de ley que debatimos hoy el artículo quince ya establece la obligación de constituir comisiones territoriales de garantías de admisión las cuales entre sus funciones

y garantizar el cumplimiento de la normativa que lo regula sin perjuicio de las funciones y competencias de la inspección

estas actividades de inspección realizadas tanto desde las comisiones de escolarización como desde la inspección educativa forman parte de la actividad cotidiana del departamento de educación y el departamento como no puede ser de otra manera

tales como cuotas de cooperativista ayudas para la congregación etcétera y en todos los casos en los que ha intervenido la inspección se ha garantizado que no se emiten cuotas diferentes de las relacionadas con las actividades complementarias y extraescolares o con la prestación de servicios

otras cuotas como las que acabo de mencionar estas aportaciones tendrán carácter voluntario y nunca se referirán a conceptos asociados con el servicio de escolarización

los pilares que definen el contenido de nuestra enmienda a la totalidad y para la que pedimos su voto a favor eskerrik asko

el otro cincuenta por ciento del sistema qué pues asegurarle la gratuidad como dice su ley nosotros hemos llegado aquí a decir que se cumpla la ley únicamente ustedes se conforman con seguir inspeccionando cuando esa inspección no es suficiente

más y que además se informe a las familias porque hoy por hoy y con el caso que ha dicho la señora ubera está demostrado que las familias no conocen sus derechos

concertado sí concertado o privado subvencionado que es exactamente igual no conocen sus derechos y resulta que esos centros deberían ser gratuitos y estamos hoy en ese debate en la gratuidad para una red y la otra

a un centro concertado y me han comentado que por matricular a mi hijo en infantil me cobran noventa y cinco coma veintinueve euros al mes

que si es bachiller bachiller que la concertación en bachiller pensaba yo que no se podía están concertados sí pero que tienen que cobrar ciento treinta y siete coma cuarenta y uno

que por el aula matinal ochenta y nueve y además me dicen que tengo unos servicios complementarios los que usted ha mencionado de sesenta euros al año haga suma y dígame si su escuela la escuela concertada garantiza el acceso a todo el alumnado

dígame qué familias pueden acceder a estos centros en igualdad de oportunidades

ha presentado un informe en gasteiz donde se dice que la brecha socio económica entre la concertada y la pública cada vez es mayor

señor pastor claro que la política es oportunidad sabe usted por qué paramos esta iniciativa porque aquí se venía a debatir una ilp

para no tapar una iniciativa legislativa popular y hoy estamos de acuerdo política es oportunidad mire

cuando lo único que estamos diciendo es que las familias que acceden a la red concertada tengan gratuidad en la enseñanza eso hemos venido a decir hoy aquí no sé por qué se empeñan en ponernos en oposición a una escuela defendemos la pública sí

que las familias que acceden a la concertada tengan gratuitos sus estudios que por eso está subvencionada hablamos de cumplir la ley en ambas redes en ambas redes señora bengoechea está de acuerdo que toda la enseñanza obligatoria sufragada con dinero público debe ser gratuita pues vote nuestra enmienda por favor no es

es una panacea es una panacea que ustedes venden cuando no es cierto todas las familias de euskadi no pueden acceder en igualdad de oportunidades a la escuela

o sea no vengamos a engañar porque es lo que ustedes pretenden nosotros defendemos la educación pública efectivamente

no estamos en contra de nadie estamos a favor de que todo el alumnado disfrute de una educación de calidad y gratuita únicamente

cuando hablan de la escuela concertada por estar subvencionada cuando no lo es porque el servicio público tiene que ser gratuito tiene que ser universal y

y por eso defendemos hoy aquí que se cumpla la ley y que la escuela concertada

bueno vamos a ver nosotros desde luego lo que no vamos a empezar es

por una razón porque intentar matar al mensajero da la sensación de que uno no está muy satisfecho con sus propios argumentos entonces por si acaso vamos a matar al mensajero

es que nadie podrá decir que este no ha sido un tema recurrente para nuestro grupo que ha estado siempre presente

de que por lo menos a mí que me toca la responsabilidad de educación es que prácticamente no he hablado de otra cosa mire nosotros defendemos la concertada claro que sí pero también la pública nosotros defendemos el sistema

íntegro lo que pasa es que parece que nadie más se preocupa de la concertada solo nosotros y se lo voy a probar en los presupuestos siempre

aumentar la financiación de la concertada para

injusta que con los mismos con las mismas obligaciones tienen menos derechos pero en los mismos presupuestos que hemos estado negociando ha habido partidas para la escuela pública

y para el conjunto del sistema ahora estoy de acuerdo parece que los únicos que defienden

concertada somos nosotros y quiero decir que lo vamos a seguir haciendo a ver

hay cosas que van más allá de las palabras que son definiciones y privado subvencionado nunca será igual que concertado de iniciativa social porque al privado subvencionado se le permite tener beneficios y al concertado de iniciativa social no es que es un problema de conceptos pero bueno no nos vamos a entretener en eso

concertada sea gratuita claro que sí toda pero claro no puedo votar lo que usted propone

supondría no solucionar el problema porque si usted

de cualquier aporte económico va a haber un cierre porque no se va a poder sostener por eso nosotros lo que hablamos

hay que conseguir mayor equidad mayor equidad porque tampoco podríamos considerar la que ha presentado el gobierno hablan del gobierno como mediador no el gobierno no es mediador ni relator ni nada de eso el gobierno es protagonista

por la sentencia del tribunal constitucional e incluso por sus propias normativas como el reglamento de la concertación de asegurar la suficiencia de la financiación

y entonces ustedes me dirán bueno vamos a ver y qué hacemos

ni hablar ni hablar pero lo que sí tenemos es un cambio de actitud mire tienen ustedes una frase que están venga a repetir la he oído mucho en los últimos veinte días que es

creo que es uno de los últimos mantras una mirada transformadora

también a la educación y primero perseguir la calidad

perseguir la excelencia financiar ambas redes

financiar ambos tipos de escolarización de manera suficiente y otro cosa que para nosotros es muy importante que es trabajar en específica en la educación específica sea en la concertada de iniciativa social sea en la pública hay criaturas hay niños hay niñas cuya educación tiene que ser específica y probablemente necesiten más recursos y tenemos que ir hacía allí y eso es lo que plantemos pero vamos

yo desde luego desde que estoy aquí y espero que con consenso y con mirada transformadora podamos llegar a acuerdos

señora macazaga quiero compartir con usted tres cifras cero el interés que han mostrado hasta ahora uno

un año desde que presentó la iniciativa y treinta

y no lo han hecho porque lo único que les interesa es el lío y revolver porque son unos oportunistas y

y dicen ser un partido plural y abierto por no decir el más plural y el más abierto pero es difícil encontrar partidos con una mentalidad más estrecha que la suya porque una vez más han dejado ver aquí al descubierto todas sus fobias porque me habla de mi escuela su escuela

sabe cuál es nuestra escuela todo el sistema todo entero

todo el sistema a diferencia de lo que le ocurre a usted

ikasleei eta familiei porque esta obcecación

este cortoplacismo les impide ver el daño que están ocasionando ustedes al sistema educativo a las familias al alumnado de la mano de determinados agentes sociales

la inspección ya está prevista y es una actividad ordinaria del departamento de educación respecto a otro tipo de cuestiones que se han mencionado nosotros seguimos

por seguir impulsando la labor de las oficinas territoriales de escolarización reforzando los mecanismos con el fin de informar orientar acompañar

apostamos porque la administración educativa siga velando porque en el proceso de acceso y admisión se garantice el derecho elección salvaguardando los principios de equidad inclusión educativa y fomento de la cohesión social

señorías presento la siguiente moción consecuencia de la interpelación que en diciembre presentábamos a la señora consejera señora tapia sobre algo muy concreto medidas del gobierno para impulsar las energías renovables el gobierno

de buscar alternativas a las energías dependientes de combustibles fósiles principalmente al petróleo en aquellos años ochenta fijaba como objetivos básicos para la política energética vasca tres principios que era la política de ahorro y eficiencia energética diversificar las fuentes de energía con el gas

renovables a lo largo de estos años tanto los acuerdos

adquiridos por los estados miembros nos van condicionando nuestro futuro energético como comunidad autónoma nos hemos comprometido también a sumar esfuerzos y a implementar medidas de apoyo para priorizar la eficiencia energética

tal y como los principales organismos internacionales relacionados con la energía han puesto de manifiesto y que nos repiten constantemente una

ahorro y eficiencia energética y en el despliegue

nosotros estamos comprometidos como comunidad autónoma por nuestras propias

y por ejemplo tenemos la estrategia vasca de cambio climático dos mil cincuenta que se aprobó en el dos mil quince es relativamente nueva y actual

dos mil cincuenta a reducir las emisiones de gases efecto invernadero

y un ochenta por ciento para el dos mil cincuenta

nos comprometimos a desvincular totalmente de los combustibles fósiles y emisiones netas cero de gases efecto invernadero

siglo a través de las energías renovables como único suministro energético

la realidad es que en el país vasco nuestro sistema energético está basado actualmente y mayoritariamente en el uso de energías fósiles entre un ochenta y noventa por ciento y el tiempo corre en el dos mil diecinueve y aquellas fechas que nos parecían muy lejanas cuando las poníamos en el papel se van acercando y no avanzamos las energías renovables suponen un porcentaje mínimo reducido del mix energético si se compara con el entorno la cuota de renovables alcanza el siete por ciento del consumo final de energía el trece

sin embargo solo representa un seis coma nueve por ciento de ese siete por ciento de la cuota de renovables implementada en euskadi y

paradójicamente somos sede de la industria puntera en generación eólica

y no la podemos implantar implantar como hacemos con otros productos

en nuestro entorno mucho más sostenible pero no lo hacemos y ahí estamos se hizo un pts de energía eólica en el dos mil dos del que se desarrolló una mínima parte

solo se implantaron ciento cincuenta y tres megavatios con cuatro parques el rechazo social que generó esta pts obligó a

que no estuvo consensuado ni con las administraciones ni con la sociedad ni con muchos agentes del país vasco

llegado a aquel punto se hizo un frenazo en seco en el desarrollo de la energía eólica como les decía la de mayor potencial de producción en el país vasco ahora

y tanto la señora consejera como el señor viceconsejero nos decían es interés del gobierno vasco impulsar un pacto entre los diferentes agentes partidos

que posibilite el desarrollo de las energías renovables la eólica en particular también el ararteko se ha posicionado y también ha hecho un informe diciendo que hay que hacer un gran pacto para impulsar la

y las energías renovables como elemento importante para esa transición esto de alguna manera ya se aprobó por unanimidad de esta cámara en el año dos mil nueve suspender el pts eólico la consecución de un consenso interinstitucional y social respecto a los planes puestos en marcha como les decía señorías

avanzado nosotros como grupo popular estamos dispuestos y nos comprometemos a pasar de la teoría a la práctica

la industria ha avanzado como les decía tenemos un tejido industrial en torno a las energías renovables muy potente más de trescientos cincuenta empresas

para el sector de renovables que no tiene nada que ver el producto del dos mil nueve con el de ahora y creo que estamos en condiciones

que el gobierno también porque así como les decía lo anuncia tanto la consejera como el viceconsejero está en disposición de trabajar por un pacto para impulsar las energías renovables

en este sentido en el que décimos que el parlamento vasco insta al gobierno vasco que una vez elaborados los documentos de análisis de inicio para la transición

se inicien los trabajos de redacción de dicho plan territorial sectorial eólico también pedimos que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a que integre el segundo pts eólico de euskadi

dos mil treinta como objetivo prioritario para conseguir incrementar la producción y el consumo de energías renovables en el país vasco también pedimos

en este punto hemos llegado a un acuerdo con los grupos que apoyan el gobierno

se ha de proceder a la consecución de un pacto en torno a la transición energética que se sustancia en esta cámara parlamentaria junto con al gobierno vasco al resto de instituciones y agentes sociales

desde el grupo elkarrekin podemos se ha presentado una enmienda que yo comparto

iniciativa de esta moción y como posteriormente tendremos un debate mucho más amplio en torno a la transición energética

creía y hemos creído oportuno dejar estos considerandos que de alguna manera nos aporta elkarrekin podemos y

renovación de la estrategia energética dos mil treinta para ese posterior debate por lo tanto coincidiendo con muchos de esos aspectos creemos que es más oportuno y así con el portavoz el señor becerra lo hemos hablado y lo hemos acordado de esa manera como les decía

esta cámara pedía que se suspenda la tramitación y que

y social respecto a la aplicación y la puesta en marcha

medidas para impulsar las energías renovables esto también fue acuerdo de las juntas generales de álava y también de las de bizkaia donde también bueno hubo este debate porque les afectaba

y por lo tanto creo que lo que estamos haciendo es reiniciar algo que se tenía que haber hecho en su momento y que no se hizo porque bueno

ha estado de alguna manera alguien me decía ha estado secuestrado de alguna manera ha estado tapado y no ha interesado avanzar

habla de un pacto es cuando desde el grupo popular hemos considerado que hay que intentarlo si se puede pues lo hacemos esa es la enmienda de transacción que hemos conseguido
presentar a esta cámara y me gustaría contar con el apoyo de todos ustedes nada más muchas gracias eskerrik asko

nuestra enmienda en este debate excede del que usted traía usted ha traído una propuesta dirigida al impulso y al desarrollo y a la planificación del desarrollo de las energías renovables

nuestro grupo considera que es un debate superado políticamente superado porque todos los grupos de esta cámara tenemos asumido a día de hoy que las energías renovables son

la cuestión a día de hoy ya no es cómo desarrollar las energías renovables sino para qué desarrollar las energías renovables si desarrollamos las energías renovables para mantener el modelo energético que impera hasta ahora

para un modelo energético nuevo que sea más eficiente más justo más solidario y más democrático argi dago beraz

no es tampoco si tenemos que cambiar la planificación

del gobierno el propio gobierno asume en esta transacción que firma con su grupo pues que efectivamente la planificación

en materia energética está completamente obsoleta el debate no es tampoco si necesitamos las energías limpias a día de hoy las energías limpias

y no solo son el futuro sino que son el presente yo tengo aquí un informe hecho por greenpeace respecto a las necesidades de euskadi y navarra

es muy superior a la demanda y nos permite plantearnos la posibilidad teórica de cubrir todas las demandas de energía no solo eléctrica en dos mil cincuenta

que las energías limpias son una alternativa es una realidad ya en abril de dos mil dieciocho la mayoría de las energías

tienen un precio muy inferior al que tienen las energías sucias

que era algo que se pensaba que no podía pasar tan fácilmente entre dos mil diez y dos mil dieciocho

de promedio han reducido su precio un ochenta por ciento por lo tanto el debate ya no es como digo si tenemos que desarrollar la energía

ineficiente injusto insolidario o caro o

más eficiente más justo y más democrático no es el momento de desarrollar ese debate comparto con usted señora lópez de ocariz y sí le agradezco su propuesta su proposición su moción en este caso

tengo que decir varias cuestiones evidentemente ante una propuesta y ante una transacción como la que han llegado nuestro grupo no se va a oponer

el plan territorial sectorial de energías eólicas como usted ha dicho el gobierno ha pasado diez años con ese plan en un cajón con ese plan secuestrado secuestrado literalmente porque nuestro grupo nada más llegar a este parlamento lo primero que preguntó fue por los informes de ese pts se nos dijo que no existían los informes

quien descubriera esos informes los informes que soportaban

y esos informes decían que euskadi tiene una capacidad de generación de energía eólica de nueve mil megavatios capaz de generar

el gobierno durante diez años sabiendo el potencial de la energía eólica guardó estos informes en un cajón y los negó incluso a la oposición esto quiere decir que el gobierno nunca ha tenido una intención real de desarrollar ni la energía eólica

económico le han parecido que eran lo suficientemente rentables como para empezar a invertir en ellas por eso no podemos apoyar esta proposición

porque en dos o tres semanas llegará aquí la ley de sostenibilidad energética la vamos a aprobar todos los grupos y en esa ley a iniciativa de eh bildu va haber una disposición que va establecer la necesidad de aprobar

y por lo tanto aunque es una iniciativa loable la suya en dos o tres semanas va a quedar obsoleta lo que sí nos interesa

ahí habla de un pacto de país habla de un pacto de país por la energía por la transición energética ahí es donde sustanciaremos este debate y ahí es donde tendremos que ver

para evolucionar hacia un modelo como digo más eficiente más sostenible más justo y más democrático nada más gracias eskerrik asko

gracias presidenta y buenas tardes a todos por empezar con la última parte señor becerra es cierto

contar las cosas enteras en euskadi ha habido un problema con la implantación de la energía eólica se plantearon en las juntas generales durante muchas legislaturas la posibilidad de poner en marcha

es un poco incoherente que seamos la comunidad autónoma modelo en el que se miren otras y además que lo exportamos el desarrollo de esta energía

que siempre que en euskadi se ha intentado poner esto en marcha ha habido una bronca política unas plataformas que se ponían en primera línea una presión a los partidos políticos

energía que han hecho que durante mucho tiempo se paralizara no es que un gobierno da igual hoy el del señor urkullu que en el dos mil nueve el señor patxi lópez tuviera eso no los ha metido en un cajón no se ha olvidado no es que no se haya querido desarrollar pero habrá que reconocer

porque aquí hay algunos que llevamos muchos años en política y efectivamente poner en marcha este tipo de energía ha sido prácticamente imposible primero porque había una confrontación de quienes creían que se estropeaba el paisaje que se estropeaba cuando en andalucía presumen de ello

pero parecía que había estado y entonces por si acaso no se podía poner y aparte de eso plataformas

que impidieron que eso se pudiera desarrollar y de aquellos barros estos lodos

yo creo que lo que está superado es que hablemos y hablemos y hablemos siempre de lo mismo pero que esto siendo la energía del presente o debiera ser del presente lo que falta son inversiones reales que hagan que más allá de los discursos políticos que lo aguantan todo y de cada uno de nuestros programas electorales llegue la hora de la verdad y esto se pueda poner en marcha

son como digo punteras y exportan no solo al resto de españa sino fuera de españa pero yo creo que en euskadi

sean el presente comparto con usted que para mí la parte más interesante del acuerdo al que hemos alcanzado con el grupo parlamentario popular es el pacto lo que parece que será un pacto de país por la energía creo que es algo de lo que se va a debatir las próximas semanas a una propuesta de eh bildu

dentro de algo mucho más global que yo creo que es la iniciativa que plantea el señor otero y que yo creo que tendremos oportunidad de debatir

como digo creo que hemos ocupado demasiado tiempo en hablar en las tribunas

incluso de algunos proyectos de ley que han llegado a esta cámara pero luego es verdad que no se han materializado en forma de inversiones reales

con esos porcentajes de los que todos conocemos y de los que nos ha hablado la señora lópez de ocariz

puesto que no llegamos ni a los límites que se nos han marcado en algunas de las directivas europeas por tanto creo

profundizar mucho más en ello reconozco la importancia de la iniciativa del grupo popular y ojala la energía eólica fuera ya una realidad sin haber esperado a entender que la energía fósil se tiene que acabar

esas empresas vascas que sean apoyadas fuera pero desde luego apoyadas dentro por mucho más de lo que yo creo que se les ha hecho y luego desde luego el partido socialista trabajará por un

y que todos formemos parte del acuerdo independientemente de quien gobierna marcando una hoja de ruta de lo que tiene que ser la política energética de este país nada más y muchas gracias

lehendakari sailburu legebiltzarkideok nos encontramos ante una moción que va a resultar efímera en el tiempo no porque no sea importante

de carga política sino porque en opinión de nuestro grupo tiene una caducidad muy marcada por un lado

porque por una parte todos los documentos de análisis que se mencionan en el punto número uno de la moción estarán disponibles en estos próximos

legales que el departamento de desarrollo económico tiene que llevar a cabo junto a los de ordenación del territorio y medio ambiente

por otro lado la ley de sostenibilidad que previsiblemente vayamos a votar

aprobaremos entre todos en dos semanas supera ya este planteamiento

solo energía eólica el segundo punto de esta moción que insta al gobierno a integrar la generación de eólica con otras renovables será a través de esta ley que digo que cito una obligación y una realidad al sumar el desarrollo

de otras energías renovables conjuntamente en el marco de un único

tal y como ya avanzó el catorce de diciembre la propia consejera tapia

el catorce de diciembre en la respuesta a la interpelación que ha dado origen a esta moción planteaba y eso engancha quizás

han utilizado hasta ahora con lo que tenemos que hacer sin demora es decir en paralelo a seguir desarrollando aquello que hemos marcado en la ley en cuanto a ahorro

en este caso del plan territorial sectorial de energías renovables creemos estamos convencidos de que debemos abrir una forma de trabajar en la que el acuerdo político primero entre nosotros los grupos que integramos esta cámara el acuerdo interinstitucional y social sean incorporado de alguna manera

yo coincido plenamente con lo que decía la señora rojo yo no creo que el segundo plan territorial sectorial de energía eólica haya estado enterrado en algún cajón por la desidia de uno u otro gobierno es decir no hay más que

de los últimos años para ver que no siempre querer es poder

tenemos que saber que ese plan territorial hasta ahora no ha salido porque ha suscitado suficientes problemas como para que todos los gobiernos que han pasado

su no puesta en marcha precisamente porque no existía consenso en esta cámara porque no existía una voluntad de llevarlo adelante si en este momento y yo interpreto por lo que oigo a todos los portavoces a todas las portavoces

si todos estamos de acuerdo en hacer eso que se viene llamando un acuerdo de país en torno al modelo energético eso que ha venido solicitando tanto el lehendakari como la consejera tapia en innumerables ocasiones y al que posteriormente nos hemos ido sumando todos en fin pues será el momento de

que debemos ser conscientes de que la viabilidad y efectividad real de un documento como este

requiere de un consenso de entidad para materializarlo que es precisamente lo que no se ha dado

ese pacto de país al que se han referido todos ustedes pero sobre todo a la necesidad de que todos juntos encaremos esa transición hacia un nuevo modelo energético que garantice desde el acuerdo interinstitucional empezando por nosotros como digo y también social

que en esta materia puedan darse es decir si queremos si realmente todos queremos deberíamos ser capaces de trasladar el consenso al que hemos llegado en la ley de sostenibilidad al resto de patas que han de sujetar

manera de voto afirmativo y otros con la abstención de apoyo a la iniciativa y solo quiero puntualizar una cosa

las energías limpias son el presente la teoría de las energías limpias en la comunidad autónoma vasca es presente la aplicación es futuro será futuro porque los números dan y aquí no hemos podido desarrollar

en el dos mil nueve por lo tanto eso es lo que queremos y para esa aplicación necesitamos el pacto por lo tanto creo que estamos

en la realidad a mí me parece muy bien teorizar filosofía

cuál va a ser ya veremos pero la aplicación no es una realidad porque no llegamos a un acuerdo y porque la aplicación de las energías renovables ha suscitado confrontación y en eso estamos la ley

de energías renovables sí señor grajales dos años dos años con un tránsito tránsito de otra legislatura dentro de dos años entonces

podamos decir que no hay que presentar una iniciativa en esta cámara

porque lo normal es que esos plazos pues se dilaten y más cuando hay un periodo de elecciones

la virtualidad la tiene claro que la tiene la tiene

la tiene y el problema como les decía nunca ha estado en la teoría

en el dos mil nueve teníamos un acuerdo de esta cámara por unanimidad y aquí estamos como entonces a mí me gustaría

que todos estemos a la altura de las circunstancias que podamos llegar a ese acuerdo y que seamos responsables

y entonces sí que podremos ser útiles para esta sociedad y tener un desarrollo de las energías renovables como tienen en nuestro entorno

miremos por donde miremos por lo tanto algo tendremos que aprender

pero no lo son no por falta de pacto sino por falta de voluntad política porque usted ha dicho que aquí en dos mil nueve se llegó a un acuerdo unánime

pero entonces si había ese acuerdo unánime por qué no se desarrolló por falta de voluntad política

de la oposición habrá habido oposición a algunos parques eólicos también la ha habido al tren de alta velocidad y dónde estamos con el tren de alta velocidad
ha habido algún problema con el tren de alta velocidad para sacarlo adelante lo que ha habido es voluntad política isiltasuna mesedez y en el tema de las renovables
no ha habido esa voluntad política eta grajales

pts eólico que es sobre lo que al final se debate hoy

en esa revisión se hicieron dos informes un ciudadano pidió esos informes el veintiuno de julio de dos mil dieciséis se los pidió al eve

documento de avance del segundo pts de la energía eólica de la comunidad autónoma del país vasco

informe de sostenibilidad ambiental del segundo pts de la energía eólica de la comunidad autónoma del país vasco realizado por arc consultoría medioambiental

cuando este grupo llego aquí los pidió por dos veces en dos ocasiones existían reitero estaban en un cajón estaban en un cajón se los dieron cuando otro ciudadano pidiéndolos por irekia los encontró por casualidad el nueve de mayo de dos mil dieciocho bueno pues

el gobierno vasco propone un gran pacto para potenciar la energía eólica qué casualidad justo un mes después de aparecer los dos informes perdidos

reitero que haya un pacto de país sobre la energía es una cuestión de voluntad política y
la clave ahora es saber si la habrá o no la habrá eskerrik asko becerra jauna euskal sozialistak rojo andreak ez du hitzik hartu

pero para que conste en acta yo no he dicho que esta moción no sea importante y que carece de carga política sino todo lo contrario

porque tiene dos límites temporales como son los documentos de análisis que se exigen en el punto número uno y la ley que vamos a aprobar en dos semanas que ya obliga

no solo de eólica pero he dicho que es importante y que tenía su carga política

para agradecerle al profesor becerra la clase magistral que me ha dado pero también

y digo si queremos debemos ser capaces de trasladar el consenso al que hemos llegado

la transición energética yo entiendo que el maestro me suspenda por no haberlas citado pero entenderá

y que nuestra voluntad de consenso abarca todo lo que es la transición hacia un nuevo modelo energético

capaces entre todos de llegar a un acuerdo a través del cual luego podamos atraer al gobierno al resto de instituciones